izateko recapitulando tenemos a un sector muy importante para nuestra economía y el empleo como es el comercio especialmente el pequeño comercio en una situación muy delicada ha sufrido en los últimos años el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de amplias franjas de la sociedad la proliferación indiscriminada y con cierto respaldo político

además se ha favorecido con normativas neoliberales como la liberalización de horarios o la desregulación de las rebajas y hemos visto también cómo la aparición del comercio electrónico ha supuesto una disrupción en el sector todo ello mientras por parte del gobierno vasco se desarrollaba una política débil y errática sin muchos recursos presupuestarios

estratégica y hasta de una elemental capacidad de coordinación con otras instituciones y con el tejido asociativo del sector

por eso hemos convocado este pleno monográfico porque queremos que las cosas empiecen a cambiar en las políticas públicas hacia el comercio y queremos sobre todo que empiece a cambiar esa evolución negativa del comercio somos lo suficientemente realistas

las limitaciones de un pleno de estas características pero humildemente aspiramos a que siendo este pleno un momento de reflexión compartida pueda ser también un punto de inflexión

hasta ahora he expuesto la situación y he valorado las causas que nos han traído hasta ella pero siendo nuestra vocación en el día de hoy eminentemente propositiva

las líneas de trabajo que podrían desde el punto de vista de nuestro grupo contribuir a empezar a revertir la delicada situación en la que se encuentra el sector

a nuestro entender las políticas de promoción del pequeño comercio deberían articularse en torno a los siguientes seis ejes primero incremento de la valoración social y política del sector segundo implementación de un nuevo modelo de gobernanza más horizontal y eficaz igualdad de oportunidades entre los diferentes canales de distribución cuarto mejora de las políticas de promoción del sector quinto modernización y digitalización

y algunas de las propuestas concretas de materialización de cada línea de intervención sin perjuicio de una explicación más detallada de algunas de las propuestas que realizaremos en la sesión de la tarde comenzaremos con el apartado de la valoración del sector del comercio

el comercio es una actividad económica esencial en su doble dimensión de generar empleo y riqueza y además suministrar a la población una serie de productos básicos

directamente esenciales para la vida el comercio de proximidad además estimula la economía local y tiene una directa aportación fiscal siendo una importante actividad económica que además tiene el significativo volumen que hemos mencionado al inicio debería como tal per se

y promoción por parte de las instituciones públicas pero además el comercio de proximidad ofrece una serie de pluses añadidos a su mera entidad económica

garantía de accesibilidad de productos básicos para toda la población solo hay que fijarse en las diferentes sensaciones que nos provoca transitar por una calle con una pujante actividad comercial o por una de esas desangeladas áreas de nueva construcción con amplias paredes tapiadas

de tiendas nos provoca una serie de sensaciones intangibles de bienestar que tienen más que ver con la pertenencia a una comunidad que con el mero consumismo

de una forma sostenida y pedagógica explicando una y otra vez que apostar por el comercio local es decir consumir en el comercio local es una decisión que redunda en beneficio y todas esto debe constituir una campaña de comunicación institucional permanente pero también es necesario que las instituciones prediquen con el ejemplo

y en sus propios presupuestos no resultaría muy coherente pedir a la ciudadanía un esfuerzo en apoyo al comercio local mientras las instituciones siguen discriminando presupuestariamente

el presupuesto actual del área de comercio en el gobierno vasco es de apenas dieciséis millónes

presupuesto que se nos acaba de presentar lo que supone una cantidad absolutamente desproporcionada

y sus problemáticas por eso creemos que duplicarla en el plazo de cuatro años sería una medida justa que además dotaría de credibilidad ante la sociedad al discurso sobre el compromiso

pero antes de reparar los efectos de la inundación necesitamos cerrar las vías de agua

a la necesidad de evitar que formatos de distribución comercial distintos al comercio local

claramente ilegítimas el pequeño comercio ha de competir

y el comercio electrónico la ciudadanía quiere que esos formatos existan y demanda su servicio no nos oponemos a su existencia

creemos que existe un sobredimensionamiento de la oferta porque se han promovido más allá de lo razonable pero pedimos eso sí que todos compitan en igualdad de oportunidades

en función de su tamaño pueden aplicar economías de escala que les permite tener unos precios más bajos así como una mayor gama de productos

ocupan áreas extensas lo que supone un coste de oportunidad territorial para la sociedad que no puede disponer de esos espacios para otras actividades o respetar su estado natural además los grandes centros comerciales pivotan sobre el uso del automóvil con lo que generan un aumento de emisiones de gasees de efecto invernadero a crear y a aplicar un mayor mantenimiento a las infraestructuras siempre a cargo del erario público más allá de esa tributación o de su tributación ordinaria

a su negativa aportación desde el ámbito de la planificación territorial y el medio ambiente y por eso proponemos la instauración de un impuesto a las grandes superficies comerciales en proporción

es un impuesto perfectamente factible ya que está en vigor en otras comunidades entre ellas nafarroa y su implantación ha pasado el filtro de los tribunales en la comunidad autónoma vasca existen cerca de ochocientos mil metros cuadrados

por lo que la aplicación de una cuota de doce euros por metro cuadrado que es la cuota que existe en nafarroa

a los diez millónes de euros anuales una cantidad nada despreciable que como ejemplo supondría que la administración ingresara una cantidad prácticamente similar al incremento que hemos propuesto en los presupuestos para comercio y hablando de centros comerciales

tras un esfuerzo ingente liderado principalmente por la agrupación euskal dendak

aprobó el pasado mes de junio una ley que regulaba y restringía la implantación de grandes centros comerciales en la periferia de las ciudades poniendo fin a un periodo

en este terreno y frenando el aluvión de proyectos que se cernían

con premeditación y alevosía y con el evidente ánimo de esquivar los efectos de esta ley el ayuntamiento de hondarribia agilizó la tramitación para en tiempo récord otorgar la aprobación inicial al macrocentro comercial que quieren instalar en el terreno de zaldunborda todo esto es un despropósito al que hay que poner fin

ni siquiera sus propios correligionarios es de destacar que al mismo tiempo pnv y psoe se han abstenido de forma calculada de rechazar el proyecto y más aun de tomar cartas en el asunto para frenarlo en opinión de nuestro grupo

el lehendakari el consejero de ordenación territorial y la consejera de comercio y turismo

que provocaría en el pequeño comercio del entorno por omisión de sus responsabilidades quiero denunciar igualmente la incomprensible y antidemocrática actuación de la mayoría de la mesa de este parlamento que de forma autoritaria ha vetado la posibilidad de que la proposición no de ley

seadebatida en pleno y la ha derivado a comisión con la evidentísima intención de poner sordina a un debate que les incomoda

en el caso de que no tengan entidad suficiente para su debate en pleno

aquí tienen señores y señoras representantes del pnv y del psoe la mesa del parlamento a los principales representantes del sector del comercio vasco algunos de la zona de bidasoa tengan el valor de explicarles ahora

no es de la suficiente entidad porque ya tuvieron valor en su momento

eta sistematiko baten baitan gauza gehiago egin behar dira consideramos necesario abrir una línea de intervención específica para impulsar el comercio local en zonas no centrales de las capitales en los olvidados barrios articulando una política consensuada con el sector para la revitalización de estas áreas secundarias

específica formación especialización zonal planes de choque en áreas especialmente desertizadas creemos igualmente importante impulsar el comercio local

donde el comercio tiene una importancia básica desde el punto de vista social incluso para el abastecimiento más básico proponemos fomentar las prácticas de singularización en los establecimientos comerciales minoristas ya que solo la diferenciación

un plus que les haga optar por ellos necesitamos facilitar la continuidad o nueva implantación del comercio singular en las zonas centrales de las ciudades para evitar el efecto clonación

y diferenciada articulando para ello una política consensuada con el sector porque ver las mismas multinacionales y franquicias monopolizando el centro de todas las ciudades nos empobrece comercial y culturalmente y además nos aburre y nos uniformiza debemos proteger a los comercios que han perdurado en el tiempo

o mobiliario reseñable creando figuras específicas de protección para las tiendas tradicionales e históricas que ayuden a la continuidad de aquellos establecimientos que se han convertido ya

que consideramos que esta tarea debe convertirse en sí misma en una línea de intervención específica y prioritaria

debe entender al igual que el resto de los sectores de la economía que la digitalización es un fenómeno irreversible que debe asumirse y entenderse a su vez como una oportunidad dentro de unos años el comercio vasco será digital o no será

que de una manera u otra también deberá ser una alternativa sino que también tendrá que integrar toda la panoplia de nuevas tecnologías y ponerlas al servicio del pequeño comercio

en las tiendas desde la gestión informática y profesionalizada a instalación de gadgets tecnológicos o el marketing digital y por supuesto

la venta a través del comercio electrónico de los pequeños establecimientos fortaleciendo las plataformas que ya existen y o creando nuevas experiencias vamos concluyendo

aunque parece que treinta minutos dan para todo pueden quedarse cortos a la hora de hacer un repaso a un sector tan amplio y complejo como el del comercio

importante sobre el marco competencial del comercio y sobre la invasión que por parte del estado se ha producido en este terreno mediante una legislación básica premeditadamente

pero en el último de los ejes a desarrollar hoy el de los derechos laborales en el sector

a la influencia perniciosa del marco estatal con respecto a los derechos de las personas trabajadoras del comercio las grandes superficies comerciales disponen de un convenio estatal este convenio permite a estas grandes superficies

que favorece a la empresa en detrimento de los derechos laborales a parte de una precarización en las propias condiciones laborales esto supone una nueva ventaja

por ejemplo a una pequeña empresa local de distribución cuyos trabajadores estén sujetos al convenio

gracias al marco estatal necesitamos un marco propio para la negociación colectiva

y condiciones adaptadas a nuestra realidad y nuestras posibilidades económicas también en el sector del comercio el sector comercial es además un sector muy feminizado sabemos que la renta media de las mujeres está a un veintitrés coma cuatro por ciento

autónoma vasca entre otros factores porque ocupan puestos menos valorados o porque quizás

están menos valorados por ser ocupados tradicionalmente por mujeres

está claro que luchar por la dignificación del empleo en el comercio traería como beneficio añadido limitar la sangrante brecha salarial

el comercio vasco el comercio pequeño el comercio local el comercio de proximidad las tiendas de toda la vida se encuentran en una situación delicada encadenando años de descensos en ventas establecimientos y empleos es hora de empezar a revertir esta situación o al menos en una primera fase de frenarla

sobre los factores que están provocando este deterioro neutralizando las injustas ventajas que disfrutan otros formatos de distribución y mejorando y renovando las políticas de promoción del pequeño comercio es un esfuerzo que parte de la concienciación social porque es la ciudadanía la que con su acción final de compra

pero para ello las instituciones han de asumir también su papel haciendo ver a esa ciudadanía la importancia y ventajas del pequeño comercio y actuando también ellas en referencia a estas políticas sectoriales

a la importancia del sector es necesario que todos los agentes que intervienen en la definición y materialización de las políticas del comercio actúen de forma coordinada compartan información y traten de remar en la misma dirección y además si es posible de forma sincronizada eso no significa de ninguna manera

tiene que haber también espacio para el debate y a veces para la discrepancia la pluralidad del tejido asociativo es parte de su riqueza

son imprescindibles incluso aunque no haya una sintonía plena hay aún mucho por hacer y eso es una buena noticia

de insuflar nuevos aires al comercio tradicional hoy hemos tratado de poner el foco en el sector del comercio y sus necesidades me consta que hoy un buen número de propuestas

y el grupo parlamentario de euskal herria bildu lo ha hecho convocando este pleno que da continuidad a una dinámica sostenida de apoyo al pequeño comercio muchas veces desde el sector del comercio

comparativo el amplio apoyo presupuestario que recibe el sector agrario que solo representa apenas un uno por ciento del producto interior bruto no negamos la necesidad de este apoyo que nos parece totalmente justo porque el sector primario aparte de desarrollar una actividad tan importante

el sustento para seguir vivos es también responsable de la gestión del medio rural de la mayoría del espacio de la mayoría del territorio

no solo como una actividad económica sino como una actividad necesaria para mantener la vida en las zonas rurales y articular el paisaje y el territorio de una manera adecuada

al sector del comercio igualmente debemos entender que las personas dedicadas al comercio son también constructores y cuidadores del paisaje del medio

de una proyección añadida es el trato que se merecen ez ditugu pertsiana itxien beltza gure kaleetan

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías nos encontramos en la décimoprimera legislatura de esta cámara y sin miedo a equivocarme puedo afirmar que es la legislatura que más hemos hablado del sector comercial minorista en esta casa y la que más veces hemos ido

por los representantes del sector comercial minorista y por eso buenos días muchas gracias una vez más por acompañarnos desde el grupo popular hemos sido

estén aquí por las iniciativas que hemos presentado en esta legislatura pero seguiremos presentando y hablando del comercio minorista cuantas veces sea necesario la actividad comercial es un sector

de los afiliados a la seguridad social del total de la economía vasca efectivamente como tantas veces nos demuestran con los datos los representantes de las asociaciones de comerciantes minoristas

en las previsiones presupuestarias del gobierno la ley de presupuestos les suele discriminar respecto a otros sectores como

treinta y uno veces mayor pero quiero hacer una puntualización el sector primario en sus presupuestos tiene una cuantía importante que no corresponde a economía o dinero de esta comunidad autónoma sino que son las ayudas

esto que en los presupuestos parece que es así hay que valorarlo en su justa medida esta cuestión es la que nos anima al grupo popular cuando hemos tenido ocasión de mejorar las partidas presupuestarias mediante

y corregir esta situación de discriminación así en el ejercicio dos mil dieciocho con nuestras enmiendas pudimos aportar un aumento del dieciséis por ciento en medidas destinadas la dinamización del sector

asociativo presupuesto vigente en este momento por la ley de prorrogados dos mil diecinueve y que este departamento se niega a cumplirla tal y como se acordó

entendemos desde el grupo popular que nuestra labor desde las administraciones debe ser cómo conseguir mejorar la competitividad del sector comercial minorista del país vasco

de manera permanente y sostenida cómo mejoramos la calidad del servicio

al cliente cómo creamos empleo de calidad

esto nos puede ayudar a tener unos mejores resultados que nuestros competidores pero además hay que conseguir este objetivo con el menor coste posible

incorporar la innovación a la actividad comercial renovación o actualización de nuestros comercios incorporar nuevos servicios o nuevos procesos

y que nos permitan mayores beneficios empresariales son tres los ámbitos a tener en cuenta cuando hablamos de mejorar la competitividad del comercio

internos propios de los comercios o empresas comerciales haciendo hincapié en aquellos factores determinantes para su actividad por otro lado están sus procesos

las alianzas empresariales y reforzando el papel de sus asociaciones y por último está el entorno los cascos urbanos que deben contribuir a que la actividad comercial

su actividad estos son los agentes los principales los que levantan la persiana los que emprenden los que apuestan por un negocio

emprendedores comerciantes en el país vasco digo casi porque realmente los datos con los que trabajos son del año dos mil diecisiete

lo que nos da hoy las estadísticas que tenemos ese es el dato que nos da eustat por lo tanto

hablo de las agrupaciones también sectoriales de asociaciones de comerciantes y por último las administraciones cada una en su ámbito la local la autonómica la estatal

contribuir a lograr una ordenación equilibrada de la actividad comercial y de los entornos

actividad también deben poner a disposición del sector herramientas

esto que es el transcurrir la coordinación y la colaboración entre los diferentes agentes

con alguna discrepancia este transcurrir normal lógico

se rompió se rompió en esta legislatura en dos mil dieciocho se cambiaron los términos se pasó de la colaboración

en la ley de presupuestos dos mil dieciocho aprobada mediante acuerdo con el gobierno vasco y el grupo popular se incorporaron partidas presupuestarias nuevas en unos casos y ampliación de cantidad

la dinamización comercial de proximidad especialmente en las zonas urbanas con una baja densidad comercial buscando unas dotaciones comerciales mínimas en estos espacios

a la actividad comercial las pueden realizar con menores costes estructurales y conocen perfectamente

partidas importantes como el programa hirigune para que las asociaciones

el tejido comercial de sus municipios ampliada de una manera importante

técnicas de dinamización comercial y para que se pudieran subvencionar los costes de gestión de las asociaciones con oficinas dado que tienen que atender

modernización del sector conseguimos aumentar como les decía antes el presupuesto de comercio un dieciséis por ciento sin embargo el gobierno

el presupuesto destinado a las asociaciones se elimina la subvención

en los demás esto no funciona así de tal manera que de lo presupuestado un veinte por ciento se queda el gobierno para su libre disposición esto no parece que es colaborar verdad

solicitada que siempre se hacía vuelta a quedarse el gobierno con un porcentaje de la partida

se redactan las órdenes de tal manera que el gobierno el departamento va haciendo una hucha de libre disposición a costa de la merma de lo dispuesto para el comercio en las partidas

que se dan a los ayuntamientos y a otros entes colaboradores

y las cambian por un convenio con las cámaras de comercio como intermediarias para el desarrollo y la ejecución del programa de formación vasca

la profesionalización del sector cámara de comercio mayoristas de industria y navegación tienen experiencia en trayectoria consolidada en comercio mayorista al retail nunca le han prestado gran atención

pero ahora parece que se han convertido en los colaboradores para todo y además obligatorio no entras en este programa o no hay más ayudas si no pasas por este convenio se ha disminuido el tiempo de los becarios en las oficinas técnicas de dinamización comercial hay una confrontación manifiesta con

los puntos por estar asociado para optar a los programas de modernización de establecimientos comerciales

de estar asociado todas estas modificaciones suponen pérdida de asociados el presupuesto de comercio ya no mira al comercio y a las asociaciones y hacen de sectoriales el eje del presupuesto dos mil veinte que lo hemos conocido

a los ayuntamientos a las cámaras de comercio a las agencias estas partidas superan con crecer a las destinadas al comercio y las asociaciones

con un comercio minorista competitivo era necesaria la colaboración del comercio

como colaboradores para ordenar la actividad y los entornos donde se desarrolla hoy sentimos que hay más interés en buscar agentes colaboradores fuera del sector como las agencias del desarrollo las cámaras que ofrecer financiación para estructuras

les vacían de contenido esto perjudica claramente el asociacionismo y la representación en los foros de decisión esto nos preocupa enormemente porque es imprescindible que el sector del comercio minorista participe en la actividad que el departamento de comercio desarrolla son los agentes

son los agentes que se dedican a poner en marcha y a ejecutar esas medidas por lo tanto si no contamos con su visión con sus aportaciones difícilmente vamos a acertar en los diagnósticos

del observatorio de comercio ikusmer como les decía del país vasco un observatorio una herramienta modelo para otras comunidades autónomas con una trayectoria

justo cuando aquí se cerraba el observatorio en navarra se ponía en marcha su observatorio calcado al de aquí copia y seña imagen de ikusmer

conocimos y ahora sorprendentemente y después de diferentes noticias en un derroche de originalidad vamos a tener por lo que veo en los presupuestos tres

y quien lo va a poner en marcha pues quién va a ser el elemento innovador por excelencia algo que hemos descubierto las cámaras de comercio que a pesar de su escasa relación tradicionalmente con el sector de comercio minorista

todo lo que se refiere al comercio minorista ahora lo copan todo

y a todo pueden optar por dar un dato miren ustedes la composición de sus plenos si voy a la cámara de álava de treinta y seis miembros dos pertenecen al comercio minorista el resto son industria de mecánica de precisión industria de transformación de metales

industria de energía y agua industria de transporte

industria química pueden ser sus actividades

unas actividades muy importantes pero son lo suyo comercio mayorista misiones de exportación y apoyo

pero la relación que han tenido con el comercio minorista todos lo sabemos ha sido muy escasa y de hecho en algunos programas que se les ha adjudicado ya hace un tiempo para ponerlos en marcha

correspondiente próxima para que les ayude a ponerles en marcha por lo tanto creemos que esto necesita una revisión importante yo no desdeño a ningún agente colaborador pero cada uno en su justa medida y me sorprende se le llene la boca diciendo que hay que afrontar la competitividad del sector comercial vasco y lo hace sin el sector o mejor dicho contra el sector

de lo contrario pasará como la campaña lanzada por el gobierno esta campaña de estos días salvar el comercio local minorista en peligro de extinción se les ha ido la mano señorías en torno

comercios que van desde productos alimenticios bebidas de tabaco que están en torno

establecimientos ochocientos diez establecimientos de equipos tecnológicos y de comunicación

mil quinientos cuarenta y cuatro artículos culturales y recreativos

a sectores especializados más minoritarios señorías cada uno de ellos merece un respeto merece un reconocimiento a su esfuerzo por mantener en pie el negocio y un agradecimiento inmenso por levantar cada día la persiana de su establecimiento

muchos días que pueden pasar casi en blanco claro estamos en un momento complicado para el sector del comercio por eso estamos aquí pero no está en peligro de extinción el comercio del país vasco según el último dato

lo siguiente es verdad como les decía que es un dato antiguo desde nuestro punto de vista y como les decía

cercano que le permite conocer bien al cliente sus gustos y sus necesidades

en los centros urbanos foco de atracción de potenciales compradores tienen una alta especialización en producto diferenciado y buena calidad de servicio la cliente habitual es bastante fiel lo que les ayuda a mantener un ingreso fijo mínimo la edad media del

entre cuarenta y tres y cuarenta y cinco años la edad media de los comercios vascos es una media de veinticinco años por lo tanto hay un porcentaje consolidado con bajo nivel de endeudamiento un comercio veterano que soporta mejor los vaivenes económicos que se puedan dar

el quince por ciento de las afiliaciones vascas por lo tanto no es bueno lanzar mensajes catastrofistas porque no es real

pues pasa sencillamente por no analizar la campaña con el sector algo que parece tan básico tan lógico

que hayamos tenido que ver en la prensa una queja de comerciantes que se han sentido

en ese eslogan podemos mirar en el comercio que tenemos aquí vecino del parlamento

persiana dice en su escaparate dice señores clientes gracias por confiar en el pequeño comercio somos el alma de nuestra ciudad pues efectivamente muchas gracias a este comercio y a tantos y tantos que hay en el país vasco que levantan cada día la persiana y atienden

como administración tenemos la obligación y la responsabilidad de colaborar con el comercio para que se puedan adaptar a las nuevas formas de ventas que establece una competencia a nivel mundial y requieren tomar medidas para que el comercio se pueda adaptar a los nuevos canales de distribución y comunicación cómo hacer su actividad más atractiva para el público joven para los futuros consumidores cómo incorporar

la pirámide poblacional influye directamente en el sector del comercio minorista y también requiere una adaptación específica por otra parte los gustos

los gastos aumentan sin piedad los alquileres los costes sociales los impuestos

está propiciando la proliferación de locales vacíos que tienen un efecto arrastre al entorno y merma el atractivo comercial en zonas que en otro tiempo estaban

todas estas cuestiones son importantes pero lo realmente urgente

minorista ante la proliferación de plataformas online

toda la información de su cliente y el comercio minorista tiene que hacer a esta avalancha que según todos los expertos la mejor fórmula para que el comercio de venta de producto físico combine

esto que ya lo oímos en alguna jornada de comercio

realmente nos queda mucho camino por desarrollar porque estamos como si dijéramos en pañales porque la venta por ambos canales

y efectivamente modifica las tendencias de compra y es un campo donde la innovación aún tiene mucho que aportar sabiendo que esto llega

la administración caso omiso a esto no hemos puesto hincapié en esto lo poco que se ha hecho se ha hecho desde las propias asociaciones

asociados pero realmente el departamento no ha tenido una línea de trabajo clara en este asunto

la autonómica la foral la local debemos colaborar para generar espacios de oportunidad y condiciones favorables para que el sector comercial minorista

en las mejores condiciones y para esto no hay varitas mágicas hay que hacerlo de la mano del sector porque el comerciante el empresario comerciante es el eje

quien gana o pierde es el comerciante la administración no es el je central de esto los agentes colaboradores de la administración

fundamental quien debe desarrollar las políticas del sector comercial minorista son los propios comerciantes y las asociaciones eso es

y por eso señorías zapatero a tus zapatos cada uno en nuestro ámbito

consejera consejero representantes del tejido asociativo de euskadi buenos días bienvenidos efectivamente estamos ante un debate interesante y espero que el resultado del día de hoy sea además productivo porque el comercio vasco se encuentra en un proceso de reconversión en un momento de cambio de modelo

a nuevos hábitos de consumo a nuevas fórmulas de distribución comercial que tienen un importante

políticas eficientes y transversales que yo espero que sepamos estructurar a través de resoluciones y acciones que cuenten con un amplio consenso en el día de hoy

para exponer las líneas estratégicas de su departamento en lo que a la dirección de comercio se refería indicó que se estaba realizando una importante labor para conseguir que este sector en proceso de reconversión y modernización pueda enfrentarse a un escenario de cambios disruptivos importantes y además de gran calado cambios que están ligados a factores como el desarrollo tecnológico el comercio online

los entornos de competencia global que obligan a gestionar con márgenes cada vez más estrechos nuevas tendencias sociales y de comportamiento de las personas consumidoras que modificamos nuestros hábitos de consumo que gastamos de otra manera

cuatro son los ejes en los que se basa la estrategia en materia de comercio del departamento del gobierno vasco con objetivos y líneas de acción concretas que se evalúan además

la gestión comercial de los entornos urbanos y la mejora de la eficacia de las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público

tanto desde la perspectiva de la consolidación como desde la perspectiva de la modernización

en el que reconversión y modernización sectorial caminan de la mano

más pequeño cuantitativamente en término de números de empresas pero más robusto y sólido cualitativamente en términos de modernización de rentabilidad y de empleo así aunque la tendencia general apuntaría en dos mil dieciocho a la estabilización del gasto comercial con matices por ramas o formatos frente a otras alternativas de gasto por parte del consumidor el modelo comercial para satisfacer ese consumo

y presenta aun un amplio recorrido los socialistas vascos hemos querido partir en este debate de un análisis objetivo

real y no intuitivo como el que plantea el informe de seguimiento del plan director de comercio dos mil diecisiete barra dos mil veinte que se realizó en el año dos mil dieciocho contrastando ese informe con las líneas de acción del departamento de turismo comercio y consumo además de con las propuestas que han venido planteando los diversos agentes del sector

poder tener una visión global de las necesidades del sector y de la coyuntura en la que nos encontramos para poder plantear en definitiva respuestas y soluciones

soluciones posibles soluciones eficaces de amplio consenso

de todas las partes de los agentes sociales y las diversas formas del tejido asociativo del sector y también de la administración pública para generar cuanto antes una tendencia de evolución favorable del sector por eso si tenemos en cuenta los indicadores marco del cuadro de mando del plan director de comercio

además son complementarias desde la consolidación del sector y desde la modernización desde la perspectiva de la consolidación del sector la reconversión estructural que viene viviendo el modelo comercial en el último decenio asociado a diferentes tendencias globales de cambio

caída del número de establecimientos pérdida de peso del empleo autónomo y de las pequeñas unidades productivas en favor de un nuevo modelo comercial con menos empresas

del gasto comercial asociada a la deriva del gasto del consumidor

un nuevo perfil de consumidor más prudente más informado concluyen este marco y estos índices concluye que se reduce el número de pequeños establecimientos

un cero coma tres por ciento y que aunque crece el empleo asalariado

disminuye el empleo autónomo un uno coma siete por ciento dicen esos indicadores que hay una lenta pero progresiva ganancia de protagonismo de las empresas más sólidas que crece el ratio de empleo por establecimiento que pasa de tres coma treinta

al tiempo que el margen comercial se consolida y mejora y pasa de un veinticuatro por ciento a un veinticinco por ciento la densidad comercial sigue situada

y sigue siendo sensiblemente superior a la densidad española y a la densidad europea y el peso del sector sobre el productor interior bruto resiste e incluso crece

vinculada a la renovación del parque comercial en su doble vertiente

en vía de emprendimiento y sucesión por un lado y las formas de venta y competitividad por otro esa evolución señala que el comercio electrónico se abre paso de manera continuada

como de la importancia que adquieren las ventas realizadas por ese canal dicho de otro modo cada vez son más

y entre ellos cada vez es mayor la proporción de sus ventas que se realiza por esa vía ya que el crecimiento de la proporción media

sobre las ventas totales es de ocho coma uno punto al año caminamos por tanto

menor densidad comercial que se va acercando a esos ratios tanto del estado como de la unión europea pero son empresas más competitivas ahora bien es verdad también que un proceso de transformación como el descrito no es sencillo la modernización y rejuvenecimiento del parque comercial resulta compleja

como de sucesión no son fáciles así el ritmo de altas empresariales del sector

decae significativamente el proceso descrito configura un momento sectorial de dualización que no está exento de efectos no deseados por ejemplo con un amplio colectivo y sin capacidad de respuesta competitiva

un considerable recorrido de caída y un reducido pero creciente colectivo de comercios progresivamente más competitivos y modernos un

vía mejora competitiva como desde la creación de proyectos empresariales de nuevo cuño por la vía del emprendimiento y estamos pues ante un proceso que vive el sector

y que hace que las políticas institucionales de emprendimiento y competitividad en sentido amplio sean las dos herramientas estratégicas de consolidación

y que sitúa la lectura espacial del mismo como un elemento clave para garantizar no solo el servicio comercial a la ciudadanía sino la calidad de vida y la cohesión social

por ello es muy interesante también conocer aunque sea de forma sucinta la evolución de las líneas de acción de cada uno de los ejes

el plan director de comercio dos mil diecisiete dos mil veinte respecto a la modernización y rejuvenecimiento del sector que pretendía transformar la imagen y percepción social del comercio prestigiarlo profesionalmente y estimular y acompañar su modernización

como vía de fondo para una progresiva actualización competitiva

la de comunicación la de emprendimiento y la renovación de instalaciones en comunicación se ha tomado conciencia de la importancia de incorporar a todos los niveles un lenguaje y una imagen

y con la transformación que vive el sector contemplando la vertiente de la innovación en cuanto a la línea de emprendimiento en el marco creciente del envejecimiento del sector

sucesión transmisión empresarial que viene ya de lejos se ha habilitado un nuevo programa o línea de trabajo destinado a apoyar toda iniciativa de emprendimiento comercial

la vía directa de ayudas a empresas y autónomos que hayan abierto una empresa comercial o hayan ampliado una existente con nuevas vías de negocio para cubrir fundamentalmente

y también la vía de la colaboración con ayuntamientos a través de subvenciones bien a estudios destinados a identificar iniciativas que favorezcan el emprendimiento o bien a facilitar el desarrollo de los proyectos ya existentes y la inversión municipal que a ellos se asocia en el ámbito de la competitividad empresarial el objetivo

la competitividad empresarial del sector a través de la mejora generalizada de los estándares de gestión la digitalización

y el refuerzo de las competencias de sus empleos y para conseguir este eje se planteaban cinco líneas de trabajo diferenciadas para abordar la competitividad

la gestión y mejora competitiva la digitalización los estudios sectoriales los proyectos singulares de cooperación competitiva el empleo y las cualificaciones y para avanzar en este eje el departamento de turismo comercio y consumo ha incidido en proporcionar al comercio vasco las herramientas para superar

programas como e commerce evolucionan y han digitalizado a más de trescientos comercios anualmente

y ofrece asesoramiento tecnológico en tres niveles para quien comienza

para aquellos que quieren implementar mejoras en su sistema y para lo que se ha venido a definir como las llamadas liebres digitales y ya están comercializándose en plataformas online se ha incorporado el módulo para empresas avanzadas

que pueden actuar además como referentes y como empresas tractoras y en este eje

resultan fundamentales para un avance en la gestión de la gobernanza que contribuya a una mejora de dichas políticas en el ámbito de la gestión comercial de entornos urbanos el objetivo es profundizar en la misma mediante el enriquecimiento y la diferenciación

para optimizar su potencial transformador y eficacia y a la vez también favorecer la percepción del territorio como espacio de convergencia de las diferentes políticas

la hibridación sectorial y dinamización comercial y la línea de la innovación y el enriquecimiento de las actividades de dinamización la hibridación sectorial

ha sido explícitamente incorporado en las órdenes de ayudas de hirigune para impulsar la innovación en las actuaciones urbanísticas y de dinamización sobre los entornos urbanos y para introducir la mirada sobre los barrios como espacio de comercio de proximidad de forma explícita y complementaria al tradicional centro

se ponen las políticas al servicio de los objetivos de desarrollo económico y social de las áreas más sensibles por ello se continúa con la apuesta por el comercio de proximidad

en nuestros pueblos y en nuestras ciudades con especial incidencia en los que los índices de desempleo son superiores a la media de la comunidad autónoma en cuanto a la línea de actividad denominada innovación y enriquecimiento de las actividades de dinamización

representan históricamente una parte muy importante de las políticas desarrolladas por el departamento de turismo comercio y consumo porque permiten hacer más visible al sector

del importante papel vertebrador que juega el comercio a nivel social a nivel también económico genera flujos de consumidores incrementa la viabilidad y la rentabilidad y favorece la animación de entornos urbanos que es un hecho que facilita además el anclaje a la población a sus barrios y a sus municipios

por el programa hirigune por la actividad de las plataformas urbanas de las tres capitales en las que el departamento de comercio a través de la cobertura del coste

tracciona una aportación municipal de los ayuntamientos similar esto genera un amplio panorama de actuaciones con un importante componente de dinamización

los convenios de colaboración nominativos con diversas entidades que cubren actividades de dinamización territoriales y o proyectos singulares en este ámbito

el objetivo era mejorar la eficacia de las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público en el diseño y seguimiento de las mismas y el refuerzo y optimización de los recursos humanos y técnicos disponibles para ello para trasladar las políticas comerciales al territorio

los recursos sobre el terreno y ecosistema asociativo y municipal la integración y convergencia de políticas y la creación y gestión de las gerencias de plataformas urbanas

a través de las reuniones del departamento de comercio que ha mantenido con los agentes del sector comercial estos han conocido el momento en el que están esas líneas de ayudas y los programas cuáles son las prioridades a futuro y cuáles serán las nuevas actuaciones a desarrollarse en colaboración con el sector el departamento ha preparado además una batería de estudios destinados a realizar un análisis de las nuevas realidades

algunos de esos estudios concretos son la situación del comercio tradicional

el comportamiento y la incidencia de las plataformas de venta online en la realidad comercial vasca

la percepción social del comercio por la ciudadanía y los estudios sobre empleo tras la creación del órgano estadístico del departamento se está trabajando en un monitor de turismo y comercio transversal

al sector de forma estructural y con una herramienta online de un uso simple a medida partiendo del análisis y la evaluación de las estrategias

y de las políticas implantadas a través del plan director de comercio dos mil diecisiete dos mil veinte y reflexionando en base a la evolución de los indicadores se establecen las líneas de acciones en los ejes estratégicos y sus modificaciones necesarias para hacer más eficaces los programas y los proyectos que afectan al sector del comercio

que ha seguido para el ámbito del sector comercial en euskadi esta cámara el parlamento vasco ha tenido también su actividad política de debate y propuesta respecto al sector del comercio

destacar el hecho de la incorporación en el primer semestre dos mil dieciocho en relación con la conclusión de los trabajos de la ponencia

y concretamente en el plan de choque las acciones que se estaban realizando desde el departamento de turismo comercio y consumo en lo que respecta a ayudas mec ayudas hirigune a asociaciones ayudas hirigune a ayuntamientos ayudas a emprendedores a empresas comerciales y ayuda a emprendimiento

además de reforzar las ayudas al emprendimiento para empresas y municipios se incorpora expresamente el proyecto de cooperación interempresarial

federación de asociaciones de comercio de margen izquierda y zona minera

que forma parte de estas acciones y así en lo que llevamos de legislatura en este parlamento hemos tratado diversos y múltiples aspectos que afectaban al sector del comercio

entre ellas en relación con las ayudas a los ayuntamientos y asociaciones de comerciantes de euskadi

teniendo en cuenta que el comercio se enfrenta a una situación de cambio disruptivo

y el comercio local tiene que tener cada vez más claramente definidas sus herramientas de competitividad y de afianzamiento por eso los socialistas vascos entendimos necesario conocer

esas herramientas que ponía el departamento para el apoyo al comercio local para el impulso de su competitividad como elemento fundamental para la consolidación del empleo

y la gestión de forma eficiente de los espacios urbanos también preguntamos

el pequeño comercio vasco ofrecía una atención cercana y personalizada a la ciudadanía

y en los últimos años este comercio que vertebra nuestras comunidades proporciona muchos puestos de trabajo además se enfrenta a amenazas con los nuevos modelos

por eso pudimos conocer el diagnóstico que realizaba el propio departamento a través de su consejero y las medidas que se iban a llevar a cabo para ayudar al mantenimiento del empleo de este sector

que forman parte del tejido comercial para tener una mayor presencia en la red y por tanto en el mundo se precisaba adoptar y adaptar

al sector y se hacía necesaria una nueva

que hagan crecer al sector en este sentido y pedíamos cuentas al entonces consejero retortillo del resultado que habían propiciado en el tejido comercial vasco

programa que ahora se pretende su continuidad a través de diversas propuestas en relación con las nuevas ayudas al emprendizaje en el sector comercial vasco

tanto de las empresas como de las personas autónomas y conocer el balance que hacía la consejera

y el balance de ese programa sin personas emprendedoras que tomen el relevo y que promuevan vías de acceso al comercio

nuestro modelo comercial un modelo cuyo principal objetivo debe ser la consolidación del empleo de calidad en el sector con un especial enfoque en el acceso

además la dinamización de pueblos y ciudades y tener como no una gestión eficiente de los espacios urbanos en el debate del

los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos presentamos una enmienda a la totalidad que no llegó a votarse el gobierno en su informe sobre el cumplimiento de iniciativas en el primer semestre

señalaba que el decreto ciento veinticuatro barra dos mil dieciocho de treinta de julio de creación del órgano estadístico específico del departamento de turismo comercio y consumo y por el que

estadístico específico para realizar las funciones estadísticas correspondientes a estas áreas se ha redefinido y está a punto de lanzarse el nuevo observatorio de comercio de euskadi

para poder disponer de indicadores y de pautas de referencia en la proposición no de ley respecto al plan territorial sectorial

de la votación de la aprobación de todos los puntos planteábamos solicitar a la mesa consultiva de comercio la designación de nuevos miembros para de esta manera y en el marco de este foro poder recoger la opinión respecto de este y otros asuntos de los sindicatos de los trabajadores de la patronal y de otros agentes del sector como el tejido asociativo que lo conforman el gobierno vasco reconociendo el valor del asociacionismo en el ámbito del comercio mantiene con las diversas asociaciones y plataformas así como con los diferentes actores

habituales que redundan en la mejora de las políticas de promoción de fomento y fortalecimiento del sector en concreto la propuesta de presupuesto planteada para dos mil diecinueve por el departamento proponía una cifra cercana al millón de euros

de asociaciones y plataformas comerciales de euskadi de esta manera los programas y las políticas de apoyo al comercio

incorporan una visión global y están desarrolladas para el beneficio del conjunto del sector el departamento de turismo comercio y consumo comunicó con fecha treinta de julio

un programa que tiene como objetivo impulsar procesos relacionados con la innovación

y promover también estrategias de colaboración a nivel municipal

y se destacaba como novedad el aumento del número de oficinas técnicas que acogerían el programa que pasaron de ser de treinta y ocho

el ocho de marzo aprobamos en esta cámara por unanimidad una iniciativa relativa a las consecuencias que la aplicación de la directiva bolkestein tiene en el comercio ambulante el departamento de turismo comercio y consumo señaló que desde la convocatoria del dos mil diecisiete

las estrategias zonales de cooperación dinamización y competitividad para que se consideren susceptibles de ayudas las actuaciones necesarias para adecuar comercialmente y las infraestructuras urbanísticas de los municipios incluyendo equipamiento urbano siempre que las actuaciones se desarrollen en áreas

y vayan dirigidas al acondicionamiento de áreas específicas para el desarrollo del comercio ambulante y ocasional ubicadas en el entorno

a las medidas especiales urgentes para el impulso del pequeño comercio vasco el acuerdo que adoptamos por mayoría en esta cámara se refería a que instábamos al gobierno vasco

en el seno del órgano de coordinación tributaria la fiscalidad vinculada al comercio en segundo lugar instábamos al departamento de turismo comercio y consumo del gobierno vasco

tienda tradicional y tienda histórica junto con los agentes del sector en la mesa de comercio de euskadi y los criterios de ayudas para fomentar este tipo de comercio

al departamento de turismo comercio y consumo del gobierno vasco a trabajar y consensuar con los agentes del sector y en el ámbito de sus competencias

de manera que junto con el gobierno del estado se puedan adoptar las medidas más beneficiosas para el comercio en euskadi permitiendo además de una efectiva conciliación y condiciones laborales dignas a las personas trabajadoras del sector comercial en cuarto lugar instábamos en aquel acuerdo aprobado al gobierno vasco

los programas las medidas y las ayudas que más consenso aúnen en el sector comercial y que se incorporen dentro de los instrumentos de planificación que se aprueben

como mínimo la media porcentual de incremento que experimente el departamento de turismo comercio y consumo

una última proposición de ley que se aprobó también en este parlamento relativa a la promoción del comercio local y de proximidad en la que se instaba a las instituciones competentes a analizar en el seno del órgano de coordinación tributaria la fiscalidad vinculada al comercio estas han sido las iniciativas que hemos debatido en esta cámara en lo que al sector comercial se refiere

que hay que hacer un llamamiento a las administraciones vascas a los diversos agentes vinculados al sector del comercio minorista y a la sociedad vasca en general para conseguir un amplio consenso

del comercio de proximidad vasco habida cuenta de su importancia en el empleo en la actividad económica y también en la articulación social del país los retos y las reconversión del sector del comercio en euskadi deben contar

al ámbito competencial establecido por ley de medidas concretas dirigidas al sector y a las administraciones públicas competentes con el objetivo de mejorar

contando previamente con la opinión de los y las profesionales del sector asociaciones sindicatos y el resto de agentes del sector del comercio así como con la de las propias administraciones desde el gobierno vasco se debe profundizar en la colaboración interinstitucional con el fin de integrar al comercio de proximidad y singular también en las estrategias de promoción turística de euskadi teniendo en cuenta su potencialidad como elemento que genera

los socialistas vascos estamos convencidos que los términos colaboración y coordinación son los principios claves para determinar la forma de trabajar de la administración con

con el sector del comercio minorista para los agentes sociales para el sector del comercio minorista con el fin de lograr también la adaptación del comercio en euskadi a los objetivos sostenible desde el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra también consideramos que entre los retos para el futuro del modelo de comercio vasco está la visibilización y por tanto

en la actividad económica comercial y de ahí que se deban impulsar y fomentar desde la administración pública en sus acciones la adopción de criterios sociales y de igualdad que primen la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres

los socialistas vascos consideramos necesario el refuerzo de las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público y la gobernanza manteniendo una interlocución

con el sector del comercio y con todos sus agentes el modelo comercial vasco debe contribuir también a la articulación social de los territorios debe aportar sostenibilidad debe aportar creación de empleo diversidad innovación seguridad a la ciudadanía vasca y creemos que hay que seguir impulsando y mejorando la complementariedad y sinergias entre las políticas de competitividad sectorial y las de dinamización de espacios urbanos

público privada también consideramos que el gobierno vasco debe trabajar y servir de mediador

para lograr una efectiva conciliación y condiciones laborales dignas

en el sector comercial debe haber una política de colaboración y coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones del comercio de proximidad contando siempre con la opinión de los y las profesionales del sector de los agentes afectados y de las propias instituciones que estamos implicadas es fundamental la sensibilización

del comercio local como la que se está llevando en la actualidad no solo por su implicación en la economía y el empleo sino porque es garante

por eso los socialistas vascos apoyamos la labor que el gobierno vasco está realizando

en la economía vasca como un sector preparado y capacitado ante la nueva coyuntura y circunstancias del consumo de nuestra sociedad

a las nuevas situaciones que se imponen en una economía globalizada sin perder en el camino los factores más positivos que tiene el comercio minorista vasco y que lo hacen singular y diferente esto no es autocomplacencia esto es autoexigencia por parte del gobierno vasco por parte de las instituciones vascas

y las soluciones sobre todo pero que sean soluciones factibles no cantos al azar de lo que pueda venir sucediendo en la sociedad o que nos haga ser más o menos demagogos todos estamos implicados todos queremos lo mejor para el sector del comercio de euskadi espero que los trabajos de hoy
llevar esa evolución favorable nada más gracias eskerrik asko corcuera andrea

egun on denoi eskerrik asko presidente andrea dar la bienvenida a todas las personas representantes de los

del sector comercial que hoy han venido a esta cámara el comercio es a una ciudad como la piel al rostro

hasta el punto en que podemos identificar el dinamismo o la decadencia de un lugar por medio de la vitalidad de unos comercios que son fundamentalmente

no son solo lugares en los que adquirir bienes y servicios necesarios para nuestra existencia sino que también dan vida a nuestras calles y plazas

al tiempo que dinamizan los barrios al incentivar la economía la movilidad y la propia convivencia es por ello que los barrios con comercios son vivos en los que apetece pasear acudir al encuentro del otro o de la otra descubrir nuevas propuestas mientras que los barrios sin comercios son espacios vacíos fríos e inseguros y precisamente por ello acude a los lugares donde hay comercios porque también allí hay personas y porque hay intercambios y porque hay

los comercios locales llevan décadas luchando por resistir ante la irrupción de nuevas fórmulas de venta primero fueron los supermercados luego llegaron los grandes centros comerciales y más recientemente el comercio electrónico y las grandes plataformas de venta por internet obligando a cuidar más

a dotar de una mayor especialización a la oferta y a mejorar la identificación y la cercanía con los clientes la irrupción de la crisis

a una política institucional de olvido del comercio tradicional en favor de gigantescos centros comerciales

en hondarribia a los que se dedican más apoyos políticos y recursos públicos ha propiciado que entre los y las comerciantes una sensación de soledad y de ausencia de una política de apoyo específico al comercio de barrio como parte

y municipios de euskadi porque además de luchar sobrevivir ante estos tiempos nuestro pequeño comercio también debe reinventarse

y actualizar su oferta comercial para hacerla más atractiva incorporando las nuevas tecnologías mejorando y adecuando

funcional desplegando campañas más imaginativas y más creativas que permitan acercarse a sus potenciales clientes y estableciendo relaciones

de fidelización que sean efectivas demasiada para unos hombros tan frágiles el sector del comercio se encuentra en una situación muy preocupante en nuestra comunidad especialmente en lo que hoy nos corresponde que es el comercio local y de proximidad mientras el crecimiento del producto interior bruto nos dice que técnicamente hace tiempo que hemos dejado atrás la crisis sin embargo el comercio vasco

sin precedentes y en lugar de percibir signos de revitalización

que indican que la situación está empeorando en los últimos tiempos así entre los años dos mil ocho y dos mil dieciocho se ha reducido en un dieciséis por ciento el número

el número global de trabajadoras y trabajadores del sector se ha reducido un dos coma ocho por ciento pero entre las autónomas y autónomos el retroceso ha sido

la pérdida de empleo se ha centrado en el pequeño comercio y en alguno subsectores

llegando incluso al treinta por ciento de los establecimientos desaparecidos en la última década hay más datos preocupantes las ventas

las asociaciones de comerciantes de este territorio ya han manifestado que

el peor de la historia para el comercio de hecho se han cerrado trescientos tiendas y las ventas están retrocediendo en la última década en bizkaia ha desaparecido cada año un dos por ciento de los comercios y en el resto de territorios la situación tampoco es muy aragüeña

se han perdido novecientos tiendas y en gasteiz casi quinientos detrás de esta situación se encuentran varios factores y razones

supuso una merma del poder adquisitivo de la población que aún no se ha revertido

por otra parte entre las medidas neoliberales adoptadas con la excusa de la crisis han entrado en vigor algunas medidas liberalizadoras en contra del comercio local

y siempre impulsadas por los partidos de derechas los mismos que dicen favorecer el emprendimiento y el empleo autónomo en tercer lugar tenemos que mencionar

en el modo de hacer las compras siendo su más claro exponente el fenómeno del comercio electrónico que tiene un crecimiento anual de un veinticinco por ciento

finalmente también hay otros factores como las políticas públicas inadecuadas que no han dado al sector el apoyo que necesitaba cuando no han sido directamente

la insuficiencia crónica de los presupuestos las malas relaciones entre las asociaciones del sector y el gobierno vasco la propia disolución del observatorio del comercio vasco ikusmer la escasa la efectividad del plan territorial sectorial

a los grandes centros comerciales o a las propias multinacionales del sector del

hay numerosos ejemplos de ineficacia que además han sido

casos también de desidia y de mala gestión por parte de nuestras instituciones en esta materia y está claro que estos problemas no se solucionarán por sí mismos y que hay que hacer un esfuerzo importante para dar la vuelta a esta situación

las asociaciones del sector los partidos y las instituciones tendremos que multiplicar esfuerzos para dar impulso al comercio local y tendremos que hacerlo

y porque su dimensión económica y social es importante de hecho el comercio tiene un gran peso en la economía vasca casi un once por ciento y ciento cuarenta mil puestos de trabajo dependen

en nuestra comunidad y solo por eso tendría que recibir entendemos un tratamiento prioritario profundo y riguroso pero además el pequeño comercio aporta otros valores añadidos a la sociedad

refuerza las redes sociales y personales y garantiza

un sector económico que es tan importante cuantitativa y cualitativamente merece y requiere una atención muy especial por parte de las instituciones

cuando se encuentra en una situación muy grave para ello el gobierno vasco aprobó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete el plan estratégico de turismo

sin embargo dicho plan recibió críticas justas y merecidas porque en su diseño ofreció pocas posibilidades de participar a las asociaciones del sector y porque en sus conclusiones no recogía más que medidas sin profundidad ni originalidad

el gobierno vasco envió el plan estratégico al parlamento con el formato de una comparecencia corriente sin dar opción a los grupos parlamentarios a hacer aportaciones y convirtiendo todo el procedimiento

por lo tanto nos parece necesaria la celebración hoy de este pleno para que entre todas pongamos sobre la mesa las ayudas y medidas concretas

necesarias para defender revitalizar y poner en valor el comercio local y de proximidad en euskadi en la actualidad en el sector comercial vasco se está dibujando un escenario preocupante donde se cierran los pequeños establecimientos individuales las tiendas de barrio familiares en favor de las grandes cadenas comerciales multinacionales zara primark decathlon media markt mercadona así como de un comercio

de dos dígitos la pérdida de empleo en el pequeño comercio

por personas autónomas y emprendedoras mediante autoempleo para convertirse

pone de manifiesto que el cierre de establecimientos influye en un modelo comercial que es necesario recuperar el del emprendimiento

ha hecho que por ejemplo euskadi haya pasado de ser el territorio del estado con un mayor número de emprendedores a estar quedándose a la cola a nivel estatal según las estimaciones de las propias asociaciones el país vasco ha perdido

diez años en estos datos cabe resaltar la paradoja de que el empleo en el comercio minorista

un uno coma veintiocho por ciento mientras que el cierre de establecimientos principalmente en las zonas rurales también aumentase un uno coma noventa y tres por ciento lo que supone casi un dos por ciento es evidente que esta situación se produce

no se tiene en cuenta la pérdida de trabajadores autónomos que son quienes regentan prácticamente la mitad del tejido comercial en euskadi

el pequeño comercio tiene un futuro delicado debido a la fuerte presión

los que no están pudiendo con esta presión y acaban lamentablemente cerrando somos muy conscientes desde nuestro grupo parlamentario desde elkarrekin podemos

y sobre todo la comodidad nos empujan a comprar en grandes superficies

hemos de devolver al pequeño comercio el papel fundamental que le corresponde

empezando por fomentar el consumo responsable y el consumo en las tiendas de barrio reforzar el comercio local ayuda

porque tanto las personas propietarias como el personal empleado en estos comercios

algunas de ellas lo son además desde hace varias generaciones

a la que conocemos y saludamos a diario que tenemos cerca y a las que nos encontramos día a día

ese resultado repercutirá en nosotros y nosotras consumir en los comercios de proximidad y fortalecer la economía es una buena fórmula para contribuir a su recuperación el dinero que invertimos en las tiendas de nuestro barrio sigue circulando por el mismo

contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro entorno próximo hay estudios que demuestran que el dinero gastado en comercios de proximidad circula en el barrio tres veces antes de desaparecer en la economía general ese beneficio revertirá en personas y familias cercanas no

crecerá de forma sustancial al activar el consumo responsable y local ya que comprar en las tiendas locales es invertir en ti mismo

su bien es nuestro aunque no lo creamos los comercios locales además animan la vida cotidiana del barrio dan ambiente y personalidad a las calles

convirtiéndolas en zonas transitadas contribuyen además a la vitalidad de las ciudades

supone ver escaparates y sorprenderse con las actividades e iniciativas organizadas por los mismos una pequeña empresa es el sueño y la ilusión de sus responsables

por sacarla adelante y por atenderla muchas de ellas han ido pasando de generación en generación de padres a hijas que han crecido en la misma tienda y que en ella han aprendido su oficio merecen la pena apoyar

y que emprende esta aventura que supone abrir un negocio poniendo en él mucho tiempo

y cariño y contribuir de forma individual y colectiva a la pervivencia de los establecimientos comerciales de toda la vida el comercio local es un auténtico motor de consumo de productos locales y fabricados en la zona nos está empezando a sorprender

sepan a tomates y de que el menú del día no se componga exclusivamente de comida recalentada en nuestro pequeño comercio podemos encontrar productos diferenciados

conocemos el origen porque vendrán de granjas huertos cercanos

o productoras locales algo doblemente beneficioso porque repercute en la reducción y el ahorro

además nos posibilita conectar con los ciclos de la naturaleza al consumir productos de temporada comida de nuestra zona

fresca y de la época en la que estamos a la vez que apoyamos a las agricultoras y productoras locales otra cuestión indiscutible que nos ofrece el pequeño comercio

auténticos especialistas que podrán aconsejarnos y asesorarnos sin ninguna prisa y cuyo conocimiento y atención aportan evidentemente un valor

esta misma política de exclusividad hace además que en la mayoría de los casos el servicio postventa sea también impecable y los comerciantes y las comerciantes nos faciliten todo cuanto esté en su mano para que salgamos de su establecimiento con ganas de volver esta forma de consumo hace además

y por decisión propia y frena el consumo compulsivo de productos que nos entran por los ojos en esas estanterías de diseño y tan estudiadamente

por desgracia los y las comerciantes locales tienen que competir

de ocio con estos grandes centros comerciales y demás comercios de

en estos días en que los medios de comunicación recogen muchas veces noticias de despidos masivos en forma de ere los pequeños comercios

olvidados en las crisis económicas la gran baza

es un menor precio en los productos que nos venden pero nos hemos preguntado alguna vez cómo logran obtener beneficios a la vez que reducen los precios tras todo el dinero gastado en publicidad y marketing empresarial para reducir sus costes

esconden unas condiciones de trabajo deficientes

precarios la explotación a productoras y agricultoras a quienes en ocasiones obligan a vender por debajo del coste de producción promueven además

mediante la subcontratación a fabricantes de países empobrecidos así es

de muchas grandes multinacionales de la distribución

nos encontramos con los pequeños comerciantes agobiados por llegar a fin de mes y con un menor margen para bajar los precios que entre otras soluciones han asumido el aumento del tres por ciento del iva para intentar no asfixiar más a sus clientes y a las consumidoras

deben ser conscientes de la necesidad de fomentar ayudar y no entorpecer la existencia de la pequeña empresa

comercial familiar sin embargo es innegable que existe una pasividad por parte de las administraciones hacia el pequeño comercio están faltos de una legislación que les ampare y les proteja de la competencia desleal

superficies porque hacen falta medidas

en el mercado en igualdad de condiciones con ellas medidas que regulen cuestiones

la concesión de licencias de apertura las condiciones económicas y financieras exigibles a los proveedores la flexibilidad en la aplicación de las normativas higiénico sanitarias la financiación bancaria las ayudas y subvenciones para el desarrollo de actividades y oficios tradicionales a punto de desaparecer etcétera y en definitiva era y es preciso disponer de una ley

que tenga en cuenta el importante papel económico y social que desempeña el pequeño comercio y que tome

supone al fin una elección consciente no solo personal

política quizá más profunda de lo que nos hayamos parado a pensar y ello es así porque ir de compras es una de nuestras actividades cotidianas

una herramienta fundamental de cambio económico social y de consumo como personas consumidoras tenemos una responsabilidad tenemos un poder podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa tenemos la oportunidad de utilizar nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover

de compra y consumo y de inversión la construcción de una sociedad más justa más solidaria y más sostenible ahí es nada

por lo tanto si todos los grupos políticos estamos de acuerdo con el diagnóstico si todas compartimos que el comercio local y de proximidad se encuentra en una situación complicada

y de pedir conjuntamente que se tomen medidas concretas que ayuden a fortalecer y dinamizar este sector y sobre todo

y es ahora en el marco de este pleno monográfico específico donde podemos y debemos consensuar resoluciones y acuerdos que realmente

la situación actual del pequeño comercio en euskadi hoy nos toca culminar un trabajo amplio y riguroso que no se puede quedar

una batería de propuestas a modo de parche elaboradas y debatidas de prisa y corriendo muy al contrario nos corresponde trasladar a la cámara un desarrollo profundo de lo que para nosotras es necesario y llevamos defendiendo desde que entramos en esta institución y de lo que muchas

durante años por eso desde elkarrekin podemos consideramos que es necesario avanzar en resoluciones cuyo objetivo sea

fomentar un modelo de ciudad basado en evitar la degradación de la ciudad consolidada y en dar más protagonismo a los barrios en el desarrollo

implicar y coordinar las intervenciones institucionales para realizar actuaciones integrales que tengan un mayor impacto efectivo favorecer la coordinación y la implicación de todos los agentes que construyen barrios municipios sostenibles y ciudades habitables en las acciones que desarrollan para favorecer sinergias mejorar la convivencia

de cara al desarrollo de las estrategias que se planteen promover además la coordinación

y el propio sector privado de forma que se propicie un sistema de gobernanza que aúne

en torno a una apuesta por el comercio local y de proximidad comprender respetar e integrar las potencialidades y particularidades locales

que responda a las necesidades sociales de cada lugar de una forma sostenible evaluar y supervisar el desarrollo de las actuaciones y plantear su ajuste y su aplicación de cara a optimizar las intervenciones

sobre las que debemos incidir desde elkarrekin podemos como ya hemos manifestado reiteradamente tanto en la comisión de turismo comercio y consumo

la importancia que tiene el pequeño comercio como dinamizador de la economía local además defendemos que este tipo de comercio

de un modelo de ciudad más sostenible que ayuda a fortalecer la cohesión social y a humanizar los barrios de nuestras ciudades en esa pelea desigual nos volcamos y nos comprometemos y esperamos esa misma actitud por parte del resto de grupos políticos

a nuestras propuestas nosotras hemos centrado las mismas

del comercio local y del barrio el fortalecimiento del propio asociacionismo y la creación y el fortalecimiento también de la red ya existente de asociaciones dentro del sector comercial y por supuesto la limitación

queríamos poner en valor era la cuestión de la accesibilidad entendíamos que hay mucho que hacer y mucho trabajo por delante en cuanto

comerciales en euskadi además y ante la aparición del comercio online entendemos que la potenciación de las nuevas tecnologías

formación a los comerciantes e incluso la realización

utilizar las nuevas herramientas y las nuevas

para acercar a las clientas y a las consumidoras los servicios comerciales era un trabajo y es un trabajo por desarrollar además entendemos que hay que tomar medidas en lo que respecta a la fiscalidad sobre todo en lo que respecta a las grandes superficies comerciales además de aquellas faciliten el emprendimiento y el desarrollo del comercio tanto local como de proximidad y las que apelan a las ayudas económicas

fortalezcan al pequeño comercio y al comercio local además entendemos que hay que ser pedagógicas y hay que apostar por el producto local

tanto en medios como en colegios o en sectores de consumidores específicos para promover sobre todo un consumo

otra de las cuestiones importantes para elkarrekin podemos es la cuestión de los horarios y de las condiciones laborales entendemos que desarrollar un sector y un sector sostenible ha de basarse empleos de calidad empleos donde las condiciones laborales sean dignas y además entendemos que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres comerciantes de las productoras de las emprendedoras y en general de la mujer dentro del sector

a que se aplique la perspectiva de género en todas las políticas que desarrollemos de cara a fortalecer el comercio local

como última cuestión estaba se ha citado antes aquí el tema

que había una situación compleja y complicada donde

con lo que ello suponía de inseguridad jurídica y que gracias a una iniciativa

fue la que promovió la aprobación de la ley de equipamientos comerciales

de junio ya que había una existente inacción por parte de los partidos que sostenían al gobierno una ley que limitaba las facultades de los ayuntamientos a autorizar centros comerciales desproporcionados en las áreas centrales de sus municipios

y de manera indiscriminada van en contra del interés general de la sociedad no solo porque no favorecen el comercio de proximidad

sino fundamentalmente porque el impacto de estas grandes áreas comerciales atenta directamente

de los municipios donde se construyen amplían y perjudica claramente a quienes viven en ellos sin embargo el gobierno municipal de hondarribi tramitó esta aprobación y sin duda se multiplicarán los problemas

tiene tráfico y situará al pequeño comercio en vías de extinción

de que estamos preocupadas ante la situación y ante estos y otros efectos negativos este proyecto va a generar por tanto los efectos que pretendíamos evitar con la ley de establecimientos comerciales y no solo lo décimos nosotras sino que desde las diferentes agrupaciones de asociaciones y plataformas por el comercio de proximidad

en decir que este tipo de modelos destruyen el doble de empleos que crean además de impulsar un empleo precario y fomentar la competencia desleal puesto que son

sino del estado además de espantar otro tipo de inversiones y hacer que esas zonas

es decir suponen un urbanismo en contra del interés general además hay que añadir

y pondría en peligro la zona que protege la propia red natura dos mil

nosotras no entendemos por qué los partidos que apoyan al gobierno aparentaron y aparentan defender al pequeño comercio ante los focos del parlamento mientras que

que se pliega a los intereses económicos de las multinacionales y fomenta un modelo de precariedad lo que supone situar intereses económicos privados por encima de la voluntad democrática de esta cámara legislativa hacemos leyes para que se cumplan hacemos monográficos para acabar con acuerdos y en resoluciones que se cumplan así que lo único que pedimos en nuestro grupo parlamentario es que todas

que hoy que se acuerden que esperemos que sean muchas sean cumplidas y llevadas a cabo y no nos pase como hace unos meses y en esa línea

es una estructura o un sector económico mejor dicho que genera riqueza y empleo pero además

son un entorno que ayuda a la socialización de nuestros ciudadanos y aporta seguridad en nuestras calles el comercio como se ha dicho es vida aporta cohesión económica social

distinta muy distinta en este momento a la del turismo que está viviendo el modelo comercial existente

y la reducida dimensión empresarial estas características

para enfrentar los profundos cambios con la agilidad y la rapidez precisas cambios que están ligados a factores como el desarrollo tecnológico

digitales que se derivan de sus ascenso los nuevos entornos de competencia global que obligan a gestionar márgenes que se estrechan cada vez más para el negocio y en tercer lugar y no menos importante

que desde luego también han llegado a la sociedad vasca el comercio tiene que afrontar varias tendencias con una estrategia que le permita utilizarlas a su favor

en el que puede manejar diferentes espacios con un golpe de clic puede ser una amenaza pero también una oportunidad

plataformas aplicaciones etcétera no solo el usuario puede acceder a comprar productos

sino que además vamos retroalimentando un círculo en que los volúmenes de datos son analizados

valor por lo tanto este puede parecer un escenario imposible para el comercio tradicional de proximidad

el pequeño comercio aporta un valor que no ha conseguido el comercio exclusivamente electrónico los clientes quieren salir socializar divertirse en las tiendas

hay que democratizar la innovación tecnológica para poder digitalizar el comercio tradicional acuerdos con asociaciones para plantear proyectos de digitalización apegados al terreno y a los distintos sectores comerciales y muy importante a las demandas concretas que en terreno plantean nuestros comerciantes son

que ya conviven desde hace más de cincuenta años cuando el negocio pequeño está cerrando por no saber o no poder adaptarse al perfil del consumidor actual

ahí es donde la acción pública puede y debe ayudar al sector del comercio debemos colaborar en modernizar y rejuvenecer el sector para su progresiva mejora competitiva favoreciendo la evolución hacía un nuevo comercio que responda a las nuevas tendencias y necesidades sociales el objetivo es la mejora de la imagen y percepción social del comercio

material junto al perfeccionamiento de las líneas de apoyo tradicionales como la renovación de instalaciones es preciso apostar por un emprendimiento renovador y trabajar también

sino mejores comercios más rentables más satisfactorios más centrados en la persona más sostenibles a través de la mejora generalizada de los estándares de gestión la digitalización la cualificación del empleo

debemos profundizar en la gestión comercial de los entornos urbanos para responder a las nuevas realidades con acciones que impulsen la innovación

favorecer la diferenciación y adaptación de las intervenciones a los centros urbanos y a los barrios

de dinamización para mejorar su impacto asimismo debemos mejorar la eficacia de las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público en su diseño

la optimización operativa de los recursos humanos y técnicos disponibles y su coordinación con el sector y el tejido asociativo así como mediante la producción y gestión de conocimiento

para propiciar un aumento de la competitividad de los negocios comerciales a través del fortalecimiento de la cooperación zonal entre empresas e instituciones con el doble propósito

analizar asimismo nuevos modelos asociativos que mejoren la gestión de los espacios comerciales urbanos y la colaboración público privada es ya una necesidad

en definitiva impulsar la búsqueda de alternativas para revitalizar nuestras zonas comerciales urbanas hiri merkataritza espazioak merkataritza erreferentzien abangoardian

debemos incentivar las sinergias entre comercio y turismo y entre el comercio y la hostelería y los servicios el comercio está en una encrucijada por los cambios en las pautas de consumo por la globalización y el rápido despliegue del comercio electrónico y aquí muchas veces parece que seguimos

en el día de la marmota como si siguiesemos en el mismo modelo comercial dual

creo que ha llegado el momento de acabar con los debates viejos con los debates de hace veinte años y encarar los retos actuales que tenemos por delante

que todos los expertos los son del pasado y que no hay expertos en el futuro pero del pasado hay que aprender y no anclarse en él

de que no es el momento de los miedos no es el momento de echar la culpa de todo lo que nos pasa a un enemigo externo es el momento de lanzar al sector

porque como dice mi amigo josep rull con el cual espero poder volver a correr lo antes posible por las calles de barcelona

que el miedo y nosotros confiamos en los comerciantes y en las muchas veces invisibilizadas mujeres del comercio de este país confiamos en su capacidad de hacer frente a los retos que tienen por delante y no será fácil pero no estarán

a las administraciones públicas a los responsables políticos nos toca impulsar la competitividad de nuestro comercio gestionar de forma eficiente los espacios urbanos

las sinergias entre el comercio el turismo la hostelería o la cultura al sector le toca afianzarse en su singularidad

innovar y ser consciente del momento en el que vive de la época en la que vivimos todo esto siempre centrado en el cliente en ese camino

es el momento de caminar juntos hacia el futuro del comercio vasco besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna taldeen txanda amaitu da

lehendakari parlamentarios parlamentarias representantes del sector del comercio egun on guztioi este pleno monográfico llega en un momento en el que como he tenido ocasión de señalar desde el departamento

en el futuro de cómo afrontemos estos desafíos de las medidas que estamos adoptando y de las que adoptemos en los próximos años dependerá el futuro a nuestro comercio el comercio vasco es un sector ejemplar del que dependen muchos elementos de gran importancia no hablamos solo de puestos de trabajo sino también de la articulación social

resultarán enriquecedoras y nos dotarán de nuevos instrumentos que se sumarán a las iniciativas que venimos impulsando desde el gobierno con el apoyo del sector

pero me gustaría que fuéramos más allá y lo convirtiéramos en un pleno monográfico a las personas que hacen trabajan y viven del comercio en euskadi también es una buena ocasión para que la ciudadanía

el modelo por el que apostamos y que pretendemos que sea el que adopte en sus hábitos de consumo y compra porque con nuestra decisión de compra decidimos

cómo queremos que sea nuestra sociedad en primer lugar quiero de manera muy breve decir dónde venimos cuál es la situación actual en la que se encuentra el comercio vasco

en dos mil diecisiete encontramos al comercio vasco en un momento complicado más allá de la crisis que había sufrido al igual que el resto de la economía

como en el ámbito de la competencia en un marco de márgenes estrechos también en lo social debido a las nuevas tendencias y comportamientos de los consumidores todo esto

de significativos agentes del sector y que dio como resultado el plan director del comercio vasco un documento que marcó nuevas líneas estratégicas para enfrentarnos a un escenario disruptivo respecto a situaciones previas con un sector en una encrucijada que señalaba la necesidad del ajuste

en estos tres años no podemos hablar de una sola tendencia ya que el sector ha mostrado cierta dualidad ha crecido el porcentaje de empresas más sólidas

de empleo por establecimiento como la inversión media en un sector estable en los grandes números en el entorno del diez coma siete por ciento

ambas tendencias son por tanto las dos caras de una misma realidad

reconversión del sector con crecimiento de comercios más modernos competitivos con más rentabilidad y que generan comparativamente más empleo por otra parte la tendencia indica que vamos a un sector más pequeño cuantitativamente en términos de números de comercio la densidad comercial por otra parte

y sigue siendo sensiblemente superior a la densidad española y a la europea ese también es un hecho diferencial

en este escenario de incertidumbre con tendencias apuntadas pero no consolidadas es donde hemos aplicado nuestras políticas

hemos impulsado la competitividad de nuestro comercio por otra parte hemos consolidado proyectos comerciales con programas y políticas dirigidas al comerciante y su entorno por último hemos favorecido la renovación del tejido empresarial con programas destinados al emprendizaje

y es que solo desde la transformación y mejora competitiva seremos capaces de hacer de nuestro comercio un sector más atractivo

en las líneas de trabajo principales que venimos desarrollando y avanzar algunas de las propuestas

en el escenario que aludía al comienzo de mi intervención con la competición de nuevos operadores transnacionales hemos realizado una reflexión sobre las líneas de digitalización del departamento que se sustentan principalmente en el programa de y en la línea de gestión y mejora competitiva a través de saltokitik enpresara

es un programa ya estructurado al que desde su puesta en marcha en dos mil diecisiete hemos ido perfeccionando teniendo en cuenta las aportaciones que nos han hecho llegar desde el sector podemos decir que en este dos mil diecinueve ya se ha convertido en una línea consolidada y cuenta sus convocatorias con una importante demanda de empresas interesadas saltokitik enpresara

habilidades de gestión y calidad que toman como referencia el modelo de gestión avanzada de euskalit nuestro objetivo a futuro en estos programas es seguir avanzando en su difusión y ampliarlos a empresas más pequeñas con mayores déficits de gestión en este ejercicio dos mil diecinueve se ha incidido en el programa emco de emprendizaje comercial

era un programa novedoso y había sido largamente reclamado por el sector en el dos mil diecinueve lo hemos mejorado

en concreto hemos aumentado un ochenta por ciento la dotación presupuestaria destinada a incrementar la implantación de nuevas iniciativas comerciales los resultados son sin duda relevantes quinientos sesenta y nueve solicitudes en su primera convocatoria de las que hemos subvencionado a doscientos veintiuno con una subvención de un millón ochocientos noventa y seis mil euros

ahora estamos en el proceso de evaluar la segunda edición en este programa y en el conjunto de las líneas del departamento se ha incorporado la perspectiva de género

en las baremaciones que posibilitan una mejor incorporación de la mujer al emprendizaje y al empoderamiento laboral en el sector comercial de hecho

la gran mayoría de las empresas subvencionadas un sesenta y nueve por ciento son entidades cuyos titulares son mujeres

sobre el papel de la mujer en el comercio y sobre el empleo del sector en el caso de la dinamización comercial de los entornos urbanos

hirigune ha sido actualizada en consonancia con el plan director y cada año refleja mejoras con un veinticinco por ciento más de actuaciones que en la pasada edición

elementos tan relevantes para la modernización y supervivencia de nuestro comercio como la creación

además apoya casi a un centenar de proyectos que dan como resultado acciones de impulso y atracción como son las ferias de navidad

también se realizó en el pasado ejercicio una profunda revisión estratégica de un programa ya maduro del departamento para consolidar y mejorar sus resultados hablo del programa

que ha multiplicado su efecto palanca en más de siete puntos sobre la inversión propia

por los sectores comerciales con mayor necesidad de apoyo todo ello como resaltaba acompañado de criterios sociales

el empleo indefinido o la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones al mercado laboral una línea en la que hemos apoyado exactamente a trescientos cuarenta y nueve empresas

y una inversión inducida de trece millónes cuatrocientos ochenta y siete mil euros en el ámbito de la formación

ha sido el de la puesta en marcha de una reformulación de nuestros programas pretendemos reforzar a futuro este aspecto con el objetivo fundamental de completar un mapa de oferta adaptado a las nuevas necesidades y realidades del sector hemos puesto en marcha el programa de formación vasca

mediante la dotación de herramientas y conocimientos que ayuden a afrontar con éxito la transformación hacia un modelo más competitivo de negocio en los comercios vascos

destinada a su lanzamiento y primeras acciones que incluirán formación a medida con seguimientos personalizados y diagnósticos de necesidades formativas entre otros aspectos se abre así en el dos mil diecinueve

el plan director de comercio apuesta asimismo por el impulso de la profesionalización del tejido asociativo buscando su adaptación a las nuevas realidades y necesidades del sector

las federaciones y asociaciones son elementos fundamentales de traslación de las políticas al territorio además hemos dado respuesta a una antigua aspiración

a las estructuras asociativas y organizaciones empresariales capaces de articular en su entorno a gran parte del sistema asociativo sectorial así en dos mil diecinueve se consolida el esfuerzo presupuestario destinado a apoyar las estructuras de personal y establecimiento de las federaciones integradas

que estamos con el sector realizando un análisis de la representatividad del asociacionismo vasco el objetivo de esta iniciativa es conocer la realidad de las asociaciones del comercio

en nuestros programas y ayudas en dos mil diecinueve también ponemos en marcha el proyecto denominado turismo de compra responsable un proyecto que pretende poner el dinamismo de la demanda turística al servicio del comercio urbano tradicional atractivo y singular

tanto su dimensión alimentaria de calidad como la identidad y diseño propio que aporta la moda y la artesanía local

este programa se apoya en iniciativas ya desarrolladas e impulsadas desde el departamento como son los programas de hemengo shopping

singular dendak o las iniciativas de promoción de los mercados

o comercio singular son casos de éxito que pueden convertirse en la semilla de mayores reconocimientos y de otorgar un estatus de protección al comercio tradicional o histórico y en este punto me detengo

por su transversalidad y por su relevancia en la gestión de los espacios urbanos por tanto hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para dar mayor visibilidad

en primer lugar hemos reconocido esta figura dentro de la orden de emprendimiento

por otra parte vamos a incluir a los mercados en el club de producto euskadi gastronomika

visibilidad que ello otorga y el próximo mes presentamos un proyecto piloto de acciones dinamización en ocho mercados con distintas acciones relacionadas con la hostelería y el turismo asimismo daremos apoyo a la celebración de dos aniversarios muy relevantes que se desarrollaran en el dos mil veinte el noventa aniversario del mercado de la ribera y el ciento cincuenta aniversario

en esta legislatura hemos realizado una importante tarea de análisis y desarrollo para ofrecer al sector y a la propia administración datos coherentes abiertos y sistematizados

hemos constituido el órgano estadístico del departamento y le hemos dotado de medios para realizar la función que le indica su propio decreto ciento veinticuatro barra dieciocho

en dos mil diecinueve los esfuerzos en este eje se han focalizado en la redefinición y lanzamiento

que presentaremos al sector antes de que finalice el año y se marca el objetivo de disponer de indicadores pautas de referencia que permitan comparativas evaluaciones

y definición de las políticas de apoyo al sector comercial las actuaciones previstas para su puesta en marcha son la elaboración de un informe anual de la situación del sector

varias encuestas de coyuntura comercial trimestrales

así como estudios monográficos de los que serán oportunamente informados estamos asimismo comprometidos con la mejora de nuestra gobernanza

y del propio plan director de comercio hemos puesto en marcha la evaluación de las órdenes de ayudas y de sus resultados para la mejora de dichas políticas

de estas evaluaciones que hemos incluido nuevos criterios y mejorado nuestros programas también con el objetivo de reforzar la interlocución y la gobernanza con el sector el departamento ha puesto en marcha cuatro foros de reflexión anuales uno por trimestre en el que realizamos análisis de actualidad en este sentido quiero destacar el primero foro en el que el departamento acercó la realidad comercial de euskadi a la secretaria de estado y un segundo foro

cámaras y federaciones analizamos el marco regulatorio básico en materia de horarios comerciales

del sector del comercio hemos hecho un especial énfasis en la comunicación este ejercicio hemos reforzado la información sobre las campañas con campañas en medios de comunicación y en redes sociales así se han publicitado las ayudas o las ayudas mec

en hacer llegar a la ciudadanía la realidad del comercio vasco y lo importante que es conservar un modelo con un enorme valor añadido insistimos en la información comunicación y sensibilización como una tarea a largo plazo el comercio de euskadi

en el pasado con la última crisis hubo momentos de alarma que afortunadamente se dejaron atrás pero que han dejado al sector afectado

la competencia se ha vuelto feroz la globalización de nuestra economía

no obstante yo confío en el comercio vasco

en su modelo de proximidad en el valor añadido que trasladan a la sociedad el comercio tradicional cumple roles de especial relevancia en una sociedad cada vez más envejecida y por todo ello con su ayuda vamos a seguir trabajando en proporcionar recursos y competencias

sino en la consolidación de apuestas empresariales con apoyo al emprendimiento por un lado y por otra parte a la preservación del comercio tradicional con tutelaje y apoyo a la transmisión empresarial especialmente en aquellos negocios históricos y con tradición desde el departamento apelamos también a las personas consumidoras y aplicamos políticas transversales que implican asimismo a kontsumobide creemos en una nueva forma de consumo que se fije

y no solo en el precio en la profesionalización en el servicio personalizado en las personas que forman parte del tejido empresarial del comercio vasco

con nuevas vías de interlocución a todo el sector reforzando nuestros programas y líneas de ayudas con los recursos que salgan de los presupuestos que se aprueben en este parlamento y con la certeza de que nuestro comercio nuestras personas comerciantes